guztioi a una hora tranquila para un tema importante que no despertará pasiones pero que es de gran pasión porque es un tema que como ya ha dicho algún otro orador por la mañana es

con ese tono y eso está bien porque nosotros ya sabíamos el grupo socialista cuando propuso este debate que era de interés ciudadano del máximo interés y que convenía hacerlo y hoy el sociómetro del gobierno vasco nos los ratifica porque resulta que

de los consultados los que creen que es el problema de mayor preocupación que ocupa a los ciudadanos en el día a día diez puntos

hace un año y muy lejos de cualquier otra preocupación entendiendo también que la segunda está relacionada con problemas económicos estamos por tanto en un día en que

se manifiesta en su máximo histórico como preocupación ciudadana por lo tanto no e suna alegría pero lo estamos haciendo bien discutiendo hoy

cuando se habla de desempleo creo que lo primero que hay que abordar es precisamente cómo abordar el empleo cómo hacer que esas personas dejen de estar en esa situación y por eso entre nuestras propuestas de resolución la primera

un plan para el empleo y la economía productiva no se trata de que las propuestas de resolución que se hagan hoy aquí y yo creo que pasa con todos los grupos

que sean todas unas ocurrencias maravillosas creo que deben de ser propuestas sólidas bien fundamentadas que busquen el acuerdo

y en eso tiene un papel importante y decisivo y una responsabilidad el gobierno

por eso este plan para el empleo y la economía productiva se presenta como necesidad cuando está finalizando el período de la estrategia de empleo que está en vigor cuando se necesita por la dureza de la situación ampliar criterios y poner aún más la carne en el asador y debiera recoger todas las aristas que permiten que se aborde

que no lo tienen para hacer esto no hay otro camino y se lo pedimos al gobierno que el diálogo social y

así lo creemos que se constituya de nuevo la mesa de diálogo social que la pasada legislatura dio muchos frutos muy buenos al reunir

en medidas que fueron muy fructíferas para evitar la destrucción de empleo y mantener una fortaleza en la economía una resistencia una competitividad y digo una fortaleza para mirar al futuro

que el gobierno debe de constituirla con carácter de urgencia y debe de liderar ese diálogo social que es inexcusable para definir

las características del plan para el empleo y la economía productiva porque es su responsabilidad pero tiene que hacerlo con el resto de agentes

pero que creo que es más de detalle pero que es importantísima que son las personas porque las personas importan

del desempleo de esta tragedia personal que viven las personas que han perdido el empleo o que no logran incorporarse por primera vez a él

que corren el riesgo de cronificar su situación cuando los jóvenes después de acabar una titulación están tres años sin trabajar han perdido el tren de la profesión para la que se habían formado cuando alguien mayor de cincuenta años se queda en el desempleo y no recupera pronto las posibilidades de

tiene muy difícil volver a él y no digamos nada

como cuando hay familias que al completo están en el desempleo cuando no entra

en comarcas con altos índices de desempleo para todas estas situaciones que son particulares pero son importantes y ya no precisamente reducidas

para jóvenes para mayores de cincuenta años para

subvencionando por parte del gobierno la contratación por parte de los ayuntamientos de personas de este tipo aún cuando sean contratos que no necesariamente tengan que tener una gran duración pero sobre todo para aquellos que están en riesgo de exclusión o que están

respecto al acceso al empleo una contratación directa por parte de las administraciones públicas es imprescindible que una persona permanezca

sabemos que provoca problemas de salud

le cuesta más volver a incorporarse al mercado laboral por eso

muy importante resaltar y es un programa que habla de empleo solidario porque

está en un pre ere está en dificultades antes de reducir plantilla es importante que se llegue a un acuerdo para reducir horas de trabajo

el treinta y cinco por ciento la administración y otros treinta y cinco por ciento la empresa y el treinta por ciento restante lo dedique a formación es una forma más barata

el desempleo desde el punto de vista personal se mantiene en actividad laboral desde el punto de vista de su dignidad de su autoestima está trabajando

solidaria introduce además un elemento que está muy alejado por desgracia en esta época de las consideraciones que rigen las relaciones laborales y las relaciones en los análisis de las empresas a la hora de mantener o no plantilla

hoy se ha hablado aquí por la mañana a veces de conceptos viejos y ese es un concepto que no solo no está pasado de moda sino que necesitamos si no queremos

no estamos dispuestos antes de seguir avanzando en temas más generales sí quiero aprovechar el día que es hoy para hablar de una medida que tenemos que proponemos que es

buscar la igualdad real en el empleo no hace falta explicar mucho todos conocemos que las mujeres en el mercado laboral no importa la cualificación generalmente

estadístico tienen está estimado un dieciséis por ciento de retribución inferior

de su mismo nivel y además por razones de ocupación familiar de abandono

se ve dificultada cuando vuelve ya no está en el primer vagón de la promoción en el empleo medidas también para evitar que eso ocurra para que esos períodos que están fuera no supongan un desfase en su promoción profesional

fundamental que no se reduzca el presupuesto al menos que se aplicó en el dos mil doce durante el dos mil trece

es evidente que es lo fundamental tenemos un buen sistema de formación profesional pero necesitamos formación en sectores emergentes formación para la internalización

y formación para la reinserción laboral de los menores de treinta y cinco años están pasando demasiado tiempo sin incorporarse al mercado de trabajo y cuando uno se incorpora

y se va al paro hay que hacer que acabe esos estudios para eso proponemos la creación de un fondo

una vez que tiene una titulación oficial una titulación

el papel de la administración es fundamental no puede la administración sustituir al mercado pero sí es un

y una propuesta que hacemos que además

está bien traída por oportunidad y es mantener el empleo público que teníamos en el dos mil doce y

consejo de gobierno de esta semana se ha aumentado la jornada

eso significa significa que disminuye los veremos que disminuye

lo que proponemos en ese caso son dos cosas que ese aspecto de ese decreto se elimine y si no en cualquier caso que se compense que se compense

el nivel de empleo en la administración pública del dos mil doce también creemos muy importante instar al gobierno vasco

actúe de forma que el gobierno de españa sepa que debe derogar la reforma laboral que está en vigor porque ha provocado el aumento del paro porque nos vamos a quedar en junio sin convenios porque diluye el papel de los sindicatos

es una desregulación que va a crear más problemas que lo que pudiera arreglar que hasta ahora no ha arreglado nada más que aumentar como decía

desempleados en euskadi este año y la desregulación no es solo la que corresponde a la reforma laboral hay una

del sistema en el que vivimos por ejemplo

entre los trabajadores y los directivos que rompe la cohesión social todos estos elementos de desregulación deberíamos

que se aborden para volver a unas reglas del juego razonables que garanticen el papel de todos en las relaciones

laborales por la estabilidad de sistema además de por las personas

proponemos que se haga en la mesa de diálogo social que deberá crearse si se aprueba esta propuesta haciendo por acuerdo entre las partes un código de relaciones laborales que al menos recoja que el gobierno vasco

del marco de la negociación colectiva que se establezcan los máximos de diferencia salarial entre las distintas retribuciones

y que los convenios en función de la situación de cada empresa incluyan un porcentaje máximo de contratación temporal algunos de los elementos

donde está sentado el gobierno que incentivar la adopción de esos criterios a las patronales y

los sindicatos proponemos también para que no haya ningún espacio

donde no se cumplan las cláusulas contractuales plenamente en los ámbitos

específico para algunos sectores o para algunas relaciones contractuales por ejemplo para vigilar la igualdad salarial entre hombres y mujeres

algunos ámbitos de la construcción eso un gobierno puede hacerlo perfectamente diseñando un plan específico de la inspección

y si nos vamos a la otra pata para generar empleo fundamental es la promoción empresarial las empresas si no hay actividad empresarial no hay productividad no hay riqueza no hay tampoco creación de empleo es decir

por lo menos tanto dinero como el año pasado en dos mil doce en formar en políticas sociales para que nadie

en el camino pero a la vez hay que incentivar la economía para

y para salir fortalecidos hacía el futuro entonces creemos que se debe impulsar una propuesta programas como el programa extraordinario de financiación de dos mil doce

son programas que tienen un efecto multiplicador que permiten reestructurar balances

facilitar que salgan de apuros las empresas

tienen liquidez por lo tanto pueden atender los pedidos inversiones

creemos y proponemos aquellos programas que vayan venciendo intensificarlos crear otros nuevos si se puede y dar resultado pero es un camino

y necesitamos promocionar a nuestras empresas ahora mismo que hay sequía crediticia con programas de este tipo

la internacionalización es otra pata fundamental

en la promoción empresarial pues hagamos en tres meses un plan euskadi para la internacionalización de nuestras empresas

la administración tendrá que buscar la manera de realizar agrupaciones de empresas del tipo que sea con la formula que sea

agrupaciones del tipo que sea para poder salir al exterior

individualmente es muy difícil por su tamaño necesitan el apoyo de la administración para hacer eso y para que se muevan aguas

para hacer lo que proponemos tenemos otras propuestas para empleo verde para el sector primario para el sector turístico

otras que no están ni en estas propuestas que están en el programa electoral y estaríamos encantados de discutirlas con cualquier grupo para ayudar a

del desempleo y voy a destacar alguna cosa de todo lo que queda que me parece que no debe quedar en el tintero una es la promoción de industrias culturales es un sector

es pequeño está muy golpeado porque es una época en la que el consumo

no es el mejor momento para ellos pero es una industria con mayúsculas

igual que las pymes programas del mismo tipo pero específicos adaptados para este sector y lo proponemos así con detalle

en cuanto a la fiscalidad que es fundamental para incentivar la contratación de trabajadores por las empresas y para disponer de recursos

quiero destacar que aparte de las aprobadas en el pleno del día quince que el gobierno vasco debería de ocuparse ya de que las juntas

empezarán a aplicarlas a incentivar esa actuación

que pueden aplicarse con facilidad pero con voluntad política si no es imposible y es en la lucha contra el fraude dedicar el cincuenta por ciento de lo que se obtenga en la lucha contra el fraude en cada ejercicio

y de la eliminación progresiva de la elusión fiscal en el impuesto de sociedades el cien por ciento para combatir también el desempleo

la mayoría de nuestras empresas con problemas de pedidos con problemas de stock aparte de problemas crediticios pues deberíamos en este año

los planes renove es otra propuesta para hacer que incentivar el consumo que

se recaude más para acabar decir que hay una forma de empleo de la que todos hablamos

en este parlamento la ley de apoyo a las personas emprendedoras y el emprendimiento es fundamental para crear empleo bien por aquellas personas que tienen esa iniciativa o bien por aquellas que en un momento de su vida con dificultades para reincorporarse

con la ayuda adecuada pueden iniciar un negocio o una empresa de cualquier tipo y para eso proponemos

que en gran medida con la propuesta que hacemos de la modernización de la administración

del objetivo que había para modernizar la administración y utilizar el gobierno abierto el open data significa un ahorro para las empresas

un ahorro de costes aparte de la utilización incluso de recursos de la administración que son gratuitos necesitamos también para el emprendimiento una formación no solo financiada

para que sean capaces de aprovechar la iniciativa de emprendimiento de crear empresas
sino una formación comarcal en la que se detecten al amparo de los planes comarcales reyes jauna amaitzen joan mesedez
al amparo de los planes comarcales se detecten los nichos de empleo que están o de oportunidad en esa comarca y dirigir el esfuerzo de formación ligado a eso para el emprendimiento gracias

gracias señora presidenta

las propuestas de resolución que este grupo ha presentado en este pleno y para las que desde ahora ya pedimos

fundamentalmente en las competencias en esta materia en la materia de empleo por parte de este gobierno nosotros no hemos presentado propuestas

legislación laboral sino que evidentemente hemos hecho nuestras propuestas referidas a lo que son competencias de este gobierno

demandamos un plan de empleo un plan de empleo que como se ha dicho aquí esta mañana llegó muy tarde

que incluso se intentó maquillar la fecha para que pareciera que duraba más sin embargo finalmente fue presentado ese plan de empleo

con la solicitud del pleno de hoy y tampoco hemos podido hacer

presentamos ese plan se han puesto en marcha no se han puesto en marcha porque como digo se ha dado por finiquitado luego muchas de las propuestas de resolución que presentamos a aquel plan se han reiterado hoy aquí la verdad es que la existencia de un instrumento de trabajo en esta materia es imprescindible y por ello

la primera propuesta que presentamos la propuesta de resolución es que se traiga a esta cámara un plan

que ese plan está prácticamente ya elaborado y que se va a presentar cuanto antes pues bien yo creo que ese plan que nosotros

y para crear empleo se debería de haber presentado ya señor consejero usted ha hablado esta mañana del respeto a este parlamento pues yo creo que

no es por reiterar debates que a este grupo no le importa debatir cuantas veces sea necesario de empleo sino porque si en lugar de tener este debate

sobre empleo lo tuviéramos sobre el plan evidentemente hubiéramos hecho propuestas de resolución a ese plan y se podría haber puesto ya en marcha pero en fin nosotros en cualquier caso lo que pedimos es que en el plazo de tres meses que es lo que nosotros hemos puesto

nosotros una de las cosas que proponemos es que se traiga

antes pues todavía mejor dentro de nuestras propuestas de resolución hemos incluído los principios que deben inspirar ese plan y las líneas generales del contenido que dicho plan debe tener y lo hemos hecho atendiendo sobre todo a

y en primer lugar tenemos los jóvenes los jóvenes que al cierre del año dos mil doce tenían un cuarenta por ciento de paro que afectaba a quince mil jóvenes activos entre dieciséis y veinticuatro

inspiradores que deben regir el plan y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar el plan precisamente es eso que se tengan en cuenta los colectivos que están en situación de especial vulnerabilidad cuando hablamos de empleo como pueden ser en primer lugar los jóvenes como son

las personas con discapacidad también debe inspirar el plan el conocimiento de las oportunidades de empleo existentes

el de poner las bases para favorecer el crecimiento del empleo el llevar a cabo un nuevo modelo de formación para el empleo y una formación

activas para atenuar los efectos de la crisis económica que se favorezca la vida personal familiar y

y el desarrollo de la carrera profesional teniendo en cuenta el mérito y la cualificación

autónoma y un apartado especial de ese plan y que nosotros en nuestras propuestas de resolución así lo establecemos debe ser el dedicado a lanbide no es que este grupo tenga una especial obsesión por lanbide pero es que en la anterior

para decir que precisamente esa transformación jurídica era la que dificultaba la elaboración de la rpt que se pusiera en funcionamiento lanbide para crear empleo pues

que pedimos es que se clarifique esa organización de lanbide para que lanbide se destine a lo que se tiene que destinar que es a la creación a la búsqueda de

administrativa y de personal priorizándose de manera inmediata como decía todos los recursos a la empleabilidad

mediante un procedimiento de calidad que permita resultados eficaces por ello nosotros queremos conocer la actividad de lanbide y pedimos que se informe a esta cámara de las actuaciones de intermediación efectuadas

que anualmente se remita a esta cámara donde se detalle la operatividad de las actuaciones ejecutadas los contratos de trabajo formalizados como consecuencia de la intervención y su adecuación con la agilidad y flexibilidad necesaria de la cambiante realidad del empleo en nuestra comunidad autónoma también solicitamos

que se acorten los plazos de gestión en las solicitudes de empleo formuladas y también solicitamos que lanbide actúe con criterios de pro actividad es decir que salga al mercado a buscar directamente las ofertas de empleo y los perfiles profesionales más demandados a través de procesos de prospección de empresas y que se profundice en la implementación de los itinerarios personalizados de inserción como un derecho de todos los desempleados

así como un registro de los servicios ofrecidos y prestados a los mismos por parte de esta y también a promover la colaboración entre los diferentes

contra el desempleo también en otro bloque en el cuarto bloque proponemos una serie de líneas de actuación para conseguir

a aquellas políticas destinadas a los colectivos que están en mayores dificultades así

en primer lugar debemos desarrollar programas de orientación laboral y de formación para las personas desempleadas

aquí su empleabilidad es muy difícil y también a personas que permanezcan desempleadas durante más de doce meses consecutivos que también ven a medida que va pasando el tiempo en el desempleo ven incrementada también directamente las dificultades para su inclusión laboral también

medidas específicas con relación a las personas con discapacidad estableciendo programas de ayudas para los proyectos generadores

muy simplista pero que realmente yo creo que es básica que es por ejemplo financiar las barreras de acceso a los centros de trabajo que no en todos eso

para estas personas con discapacidad otro grupo de personas serían aquellas que están en riesgo de exclusión para las que creemos que se

formativos destinados a los mismos y crear un portal de orientación en la comunidad autónoma del país vasco euskadi orienta dotándolo de instrumentos de orientación

de la carrera profesional además también como se ha dicho aquí las mujeres y dado el día

destacarlo las mujeres todavía somos un grupo que no contamos con igualdad a la hora de acceder al mercado de trabajo y por ello se deben de tomar medidas

que permitan adoptar horarios flexibles y de conciliación de la vida familiar y profesional medidas dirigidas a la contratación de personas desempleadas

por maternidad medidas destinadas a conseguir la igualdad entre y mujeres y dentro de las mujeres cómo no hay que hablar de las mujeres víctimas de violencia de género respecto de las cuales hay que llevar a cabo programas de empleo prioritarios y por último me referiré al grupo al que me

de la intervención que es el empleo joven que debe de ser merecedor de una atención especial dentro de ese plan que como decía solicitamos se traiga a esta cámara el parlamento vasco así desde aquí queremos pedir al gobierno vasco la incorporación a itinerarios formativos a jóvenes en situación de desempleo que abandonaron tempranamente sus estudios

a desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los jóvenes sobre sus derechos y deberes laborales en colaboración con los agentes sociales a llevar a cabo un plan

a los jóvenes que gire sobre dos ejes de acciones fundamentales primero a colaborar con el sector privado y la sociedad civil para mejorar las posibilidades de desarrollo profesional y personal de los jóvenes en euskadi y por otra parte que se integren iniciativas y medidas ya existentes

que optimice los resultados y el uso de los recursos disponibles además creemos que se debe

de aquellos jóvenes que lo deseen y que están fuera y para ello establecer para su traslado a euskadi y también para que priorizando sus necesidades este colectivo pueda ser prioritario en el plan de vivienda de esta legislatura también creemos que debemos estar muy pendientes de los fondos de lucha contra el desempleo juvenil por parte de la unión europea para

todas sus potencialidades y a desarrollar la estrategia de emprendimiento y empleo joven en coordinación con el resto de administraciones públicas

también creemos que aquellos jóvenes que hayan concluido su formación debe de promoverse que tengan cuanto antes una primera experiencia profesional

en la línea en lo establecido en la garantía juvenil europea con relación a la formación de los jóvenes también creemos que se debe incrementar el número de procesos de formación certificable y el reconocimiento de experiencia

de cualificación en las herramientas tecnológicas con relación a las ayudas de empresa que creemos que en ese plan deben de ser contenidas creemos que también deben estar dirigidas a estos mismos objetivos creemos que se debe

de implantación de medidas de teletrabajo que faciliten el acceso y mantenimiento del mercado de trabajo a aquellas personas que estén en algunos de los grupos que yo

prioritaria como pueden ser como decía las personas en riesgo de exclusión

mujeres que necesitan incorporarse al mercado laboral o bien mantenerse en el mercado laboral que puedan por ello conciliar la vida laboral y familiar o porque tengan

mayores y también queremos en esta línea proponer tenemos una propuesta que es

del cheque joven es una iniciativa que creemos que fomentara el empleo estable mediante la contratación indefinida y a tiempo completo ya sea bien a tiempo completo parcial y que asegura al empleador el cobro de la cantidad consignada si realiza una contratación indefinida o a tiempo completo parcial con su titular

al joven en aspectos como actitud formación nivel cultural habilidades disponibilidad para el empleo confiriéndole de esta manera una calificación en su escala de empleabilidad

programas de fomento de la internalización de nuestro tejido empresarial plan de la competitividad del comercio minorista o programa del uso e implantación de energías renovables

y comunicación pero el plan no debe ser un documento que se quede ahí sino que debe ser un documento que debe de ser continuamente del que se debe informar y que debe de ser valorado por eso también incluimos un apartado el sexto destinado precisamente a eso a valorar y a dar a conocer todas aquellas medidas de este plan

es la elaboración de un mapa de empleabilidad con distribución territorial por zonas de empleo porque todos somos conscientes de que desde luego euskadi es muy diferente igual que es muy diferente en muchos aspectos desde luego en el empleo también lo es lo es

y lo es también en cuanto a las cualidades profesionales y de formación de las personas de esos distintos territorios por tanto creemos que ese mapa de empleabilidad que luego puede servir para llevar a cabo planes específicos

es muy importante también hacemos propuestas en materia de formación profesional porque creemos que la formación profesional es

de cara a conseguir una mayor empleabilidad que creo que es el objetivo de todos así

y vincularlos con la oferta de formación profesional y dentro de medidas proponemos la constitución de una beca salario dirigida a compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación al estudio de las personas solicitantes menores de veintiséis años y que en los centros educativos

del alumnado así como que se establezcan proyectos piloto en el campo de la formación

la formación intercambio de expertos entre empresas entre centros educativos y empresas con especial atención a las que tengan un carácter innovador en alguna de las fases del proyecto ya se ha mencionado aquí pero nosotros también lo incluimos en un apartado porque lo consideramos muy importante y es el desarrollo de la ley que se aprobó

que aumenten el número de personas emprendedoras en la sociedad de la comunidad autónoma mediante programas específicos de difusión y formación porque nosotros creemos que sobre todo

son las empresas y sobre todo y más en nuestra comunidad autónoma las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores también incluimos una serie de propuestas referidas a la administración pública porque creemos que la administración pública no solamente cuando contrata directamente sino cuando lleva a cabo contrataciones indirectas debe velar por el mantenimiento de las condiciones laborales el mantenimiento del empleo

de velar porque las empresas con las que contrate mantengan esas condiciones laborales y por último también señalar que exigimos que se continúe con la prevención de riesgos y salud laboral con el objetivo de promover la salud laboral combatiéndola hasta su máxima

y es nuestra primera medida solicitamos que se traiga a esta cámara cuanto antes como herramienta necesaria imprescindible para luchar contra el desempleo con relación a las propuestas del resto de los grupos evidentemente en las que tienen que ver con la acción de este gobierno en algunas estamos de acuerdo y por lo tanto votaremos favorablemente pero ya les anuncio desde aquí que por ejemplo con relación a las medidas fiscales pues nosotros vamos a votar desfavorablemente yo comprendo que hay algunos grupos que no pierden la ocasión para una y otra vez aunque vean

cámara no sea competente aprovechen cualquier resquicio para volverlas a presentar pero evidentemente

tienen la oportunidad de presentarla pero la contestación

presidenta en primer lugar comunicarles una buena noticia y es que voy a ser bastante más breve que los portavoces

prácticamente todo lo que tenía que decir lo he dicho durante la mañana y ahora lo que hemos hecho ha sido plasmar en nuestras propuestas de resolución

discurso y de todo aquello que hemos planteado a lo largo

finalmente hemos planteado diecinueve propuestas de resolución tengo que decir que ha sido un interesante debate y que nosotros tenemos la esperanza de que este debate y estas propuestas de resolución que finalmente se van a aprobar

salir de la crisis cuanto antes incentivar la actividad económica crear empleo y

todos los ciudadanos y especialmente a aquellos ciudadanos que se encuentran en peor situación agradecimiento también a los grupos con los que hemos podido o hemos tenido la posibilidad de conversar sobre la materia

transar algunas cuestiones

como decía diecinueve propuestas de resolución resumen perfectamente lo que nosotros hemos defendido por la mañana la segunda de ellas lo que planteamos es instar al gobierno vasco a elaborar unos presupuestos para el año en curso cuyos

de calidad y sin recortes la generación de actividad económica el apoyo a los emprendedores los autónomos y las empresas y la creación de empleo estable y de calidad

coincidimos con otros grupos en la necesidad de que este parlamento inste al gobierno central al gobierno de españa a derogar la última reforma laboral

alto y claro y expresarlo también hoy aquí en esta tarde que no estamos en absoluto de acuerdo con esa reforma laboral planteada por el gobierno de españa que únicamente ha traído

y menos derechos sociales hemos llegado a una transaccional con el grupo nacionalistas vascos respecto a la necesidad de impulsar un plan de redimensionamiento y racionalización del sector público

del número y volumen de los entes sociedades y fundaciones con participación directa o indirecta de la administración general

al menos por parte de uno de los grupos siempre se cede algo y es lo que hemos hecho nosotros pero en general nos alegra haber podido firmar esta transaccional

vascos para instar al gobierno vasco a impulsar un plan de redimensionamiento y racionalización del sector público hay alguna otra propuesta de resolución relacionada a la necesidad de impulsar el desarrollo de la administración electrónica y a simplificar los trámites burocráticos que aún existen para la creación

y nos ha sorprendido gratamente a un acuerdo transaccional con el grupo nacionalistas vascos en relación a la defensa de un contrato único indefinido hemos modificado lo que en un primer momento planteábamos nosotros pero sí que hemos llegado a una transaccional

este parlamento plantee como se dice ahí al gobierno de españa la necesidad de valorar la implantación del contrato único indefinido nos alegra esta transaccional y esperamos el voto del resto de grupos medidas relacionadas con la conciliación laboral

una propuesta de resolución para potenciar y mejorar las políticas activas de empleo un acuerdo también transaccional con el grupo nacionalistas vascos respecto a la necesidad de incrementar

y a lanbide la necesidad de intensificar las políticas de prevención de riesgos laborales el apoyo al emprendizaje a la internacionalización

en ninguno de sus departamentos porque consideramos que es algo fundamental y es la base de nuestro futuro dos

la fiscalidad una para instar al gobierno vasco a impulsar una reforma integral del sistema fiscal para hacerlo más justo y progresivo y para poder obtener recursos

en esto no ha sido posible transar nada con el grupo nacionalistas vascos y otra también para defender y pedir al gobierno vasco que impulse un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal nosotros estas dos medidas nos parecen ciertamente interesantes

en el debate del día de hoy pedimos también al gobierno vasco un plan de choque por el empleo y un plan de reactivación económica y finalmente le instamos a abandonar los proyectos de obra socialmente innecesarios o económicamente insostenibles

y priorizar las inversiones productivas e infraestructuras que sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos

y la actividad económica y también hemos incluido algo sobre lo que no hemos dicho nada hoy por la mañana pero se centra en

reconocer la importante labor llevada a cabo para el desarrollo económico de euskadi de todos los empresarios autónomos y profesionales que durante décadas sufrieron la persecución la extorsión y el acoso de la banda terrorista eta

respecto al resto de propuestas de resolución o a las propuestas de resolución del resto de grupos no voy a analizar ni mucho menos una a una pero sí que

muchas de las planteadas por los diferentes grupos son perfectamente asumibles y por lo tanto recibirán el voto afirmativo de upyd lógicamente no de todas pero sí de bastante de ellas porque son propuestas que entendemos nosotros son

para poder salir de la crisis cuanto antes nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andreak dauka hitza

etorkizuna gurea da eta en el dos mil once el gobierno vasco

elevando el tiempo mínimo de empadronamiento y reduciendo las cuantías la diputación foral de gipuzkoa

mínimo complementario para no crear situaciones de desprotección un total de setecientos tres personas que el gobierno vasco dejó y deja fuera del sistema de protección

lo suficiente a la ciudadanía nosotras por lo menos lo intentamos

desea un cambio radical en las políticas públicas quieren que seamos originales que implementemos propuestas valientes para salir de esta espiral mercantilista que condena a mucha gente a la pobreza no es suficiente con remodelar o maquillar el sistema

total y con ese objetivo hemos presentado cuarenta y tres propuestas de resolución con dos principios claros repartir el trabajo que ya existe que significa repartir de manera justa la riqueza y ese trabajo que ya existe convertirlo

empleo de calidad todo ello confluye en un punto otro modelo socioeconómico

y no en los mercados en ese modelo eh bildu quiere poner sobre la mesa conceptos que en esta cámara no se han abordado suficientemente ámbitos laborales

atención interesada o desinteresadamente y esta coalición quiere poner ese ámbito en el lugar que se merece hablamos de las actividades del cuidado

y consolidación como actividad porque actualmente el sistema nacional de cuentas no contabiliza el trabajo doméstico y el trabajo dedicado al cuidado de las personas dentro de la familia menores mayores y personas dependientes

el trabajo que dedican mayoritariamente las mujeres dentro del hogar

hortaz hitz egiten dute gure ebazpen proposamenek una de nuestras premisas es la de que se tenga en cuenta también el reparto del trabajo no remunerado y la de que se tomen medidas y en aras a la conciliación familiar y laboral

para que se potencie la actividad del cuidado como actividad económica que se regule como tal

de este país al crecimiento económico y no ha sido debidamente reconocido proponemos que se realice un estudio sobre la dedicación del tiempo al trabajo remunerado como no remunerado y mujeres y se puedan tomar medidas necesarias en aras a lograr un reparto equitativo

y teniendo en cuenta que la ley de igualdad nos parece insuficiente pedimos que por lo menos se cumpla la siguiente obligatoriedad

elaboren un plan de igualdad y lo desarrollen es decir no únicamente que lo elaboren que además lo lleven a cabo y lo desarrollen que muchas de estas empresas no lo están haciendo

consideramos que es conveniente que se revise esta obligatoriedad para empresas de menor tamaño sobre la necesidad de repartir el trabajo

implementar el contrato de relevo a los sesenta años así como adecuar la edad de jubilación en determinadas profesiones por ejemplo las del cuidado a dependientes la pesca la construcción también hemos querido incluir la idea de la precariedad laboral en nuestro discurso

se debe acabar con el mileurismo y el submileurismo proponemos un salario mínimo

de la pobreza para poder satisfacer las necesidades vitales dignamente no hemos querido olvidar la necesidad de avanzar

de relaciones laborales y de protección social necesitamos un marco propio que nos permita diseñar nuestro propio modelo

se acentúa teniendo en cuenta que el último eslabón de las imposiciones de los mercados es el gobierno vasco los mercados dictan bruselas se reitera madrid impone y el gobierno vasco el último eslabón acata sin rechistar

volver la mirada a quien está en lo alto de ese eslabón no hay nadie que se fije y se centre en las personas

de unos pocos y no de beneficio social hay que cambiarla

queremos la soberanía plena para romper con esos eslabones y mientras tanto exigimos al gobierno vasco que rechace las imposiciones y deje su actitud sumisa

vemos que no se gestionan eficazmente la gestión de la rgi ha saturado a lanbide impidiendo el diseño

políticas que ayuden a la empleabilidad de las personas es necesario por lo tanto fortalecer el papel de las personas orientadoras diseñar programas de formación

una revisión en el funcionamiento de lanbide abogamos también por el fortalecimiento del sector público de un sistema público de calidad

la gestión directa pública de servicios como pisos tutelados

psicosocial desde eh bildu entendemos que la administración pública

en la generación de empleo de calidad siempre teniendo en cuenta la rentabilidad social de cada inversión pública que se haga claro hoy en día

proyectos en los que se gastan ingentes cantidades de euros y con ninguna rentabilidad social por eso para eh bildu hospitales o residencias son estratégicas pero un tren que va de ningún sitio a ninguna parte no aumentemos el empleo público

aseguremos un empleo de calidad desde la administración pública por otro lado nos preguntamos qué miedo hay a apostar verdaderamente por el primer sector la agricultura y la ganadería

eta euskera gure kultura uztartzeko como ven tenemos

casi tantas buenas palabras como tiene el resto de grupos aunque ustedes nos superan con esas declaraciones de buenas intenciones

teniendo en cuenta que el pse el pp y el pnv ya habéis tenido oportunidades para demostrarnos que podéis pasar de las palabras a los hechos

y de momento conociendo lo poco que conocemos sobre por dónde van a ir los presupuestos pocas esperanzas nos quedan

con todas las personas que se encuentran en desempleo con las trabajadoras de aquellas empresas que se encuentran en ere

comarcas con mayores tasas de desempleo de la comunidad como son ezkerraldea y enkarterri

desde el primer momento trabajando en el plan de empleo lo sabemos el lehendakari en el discurso de investidura así se comprometió conocemos que el hecho de plantearse este monográfico de empleo

sus conclusiones en el plan en su plan aún así desde euzko abertzaleak instamos al gobierno a agilizar los trabajos de elaboración de un programa de choque a favor del empleo que tenga entre sus objetivos favorecer el empleo juvenil potenciar la integración socio laboral de las personas más desfavorecidas facilitar el emprendimiento y el autoempleo y activar la inversión

y las obras intensivas en creación del empleo esta es la primera de nuestras propuestas porque las personas construimos país día a día por ello no solamente instamos en este sentido al gobierno también instamos al resto de las instituciones a fomentar la inserción laboral la empleabilidad especialmente de la juventud sería nuestra segunda propuesta es necesaria una estrategia de empleo plurianual que contemple entre sus ejes de actuación prioritarios la financiación y el apoyo

somos plenamente conscientes que el mantenimiento del empleo es de difícil consecución

negociación colectiva y concertación social entre las instituciones públicas y los agentes económicos y sociales es importante para euzko abertzaleak poner en marcha este plan un plan

entendemos complementario al plan por el empleo un plan de reactivación económica basado en la inversión la innovación y la internacionalización

también es importante para nosotros reclamar la transferencia en la gestión de las políticas pasivas de empleo diálogo consenso negociación instamos al gobierno a trabajar

en la consolidación de un marco vasco de relaciones laborales un sistema vasco de relaciones laborales que sea fruto del diálogo social y que facilite el equilibrio

impulsar el diálogo social y la participación activa de los agentes sociales promover la participación de los y de las trabajadoras en las empresas como vía de mejora

de la competitividad e implicación en relación a lanbide como ya se ha comentado

señor maneiro hemos transado una enmienda en donde en orden a desarrollar lanbide hacia aquellos ámbitos que son prioritarios en su actividad

en la intermediación y en la empleabilidad de las personas

en la detección de necesidades e incrementando la dotación destinada a políticas activas de empleo respecto a la ejecución presupuestaria

en este ámbito instamos al gobierno a fortalecer y poner en marcha a

orientados a personas jóvenes impulsar iniciativas orientadas a facilitar el retorno perdón a euskadi de jóvenes que aporten su formación y experiencia y saber hacer esos jóvenes que

fuera proponemos establecer programas específicos de apoyo a jóvenes en empresas vascas

o empresas extranjeras con sede también en euskadi será prioritario que estos programas estén orientados a sectores de futuro y de alto potencial de crecimiento

inserción establecer medidas consideramos tremendamente importante establecer medidas específicas de apoyo a la constitución

somos conscientes de que es importantísimo y así en este sentido también instamos a nuestro gobierno a reforzar el tratamiento referido a los centros especiales de empleo de forma específica y articular medidas de apoyo

por otro lado también proponemos promover iniciativas que faciliten promuevan

formación como uno de los ejes fundamentales dentro de la empresa instamos al trabajo conjunto entre los departamentos implicados

promover planes específicos adaptados a las realidades territoriales de las zonas que resultan más desfavorecidas atendiendo así a las particularidades de cada entorno y promoviendo la participación de los agentes y entidades del entorno en la planificación de los mismos impulsar

la puesta en marcha de una estrategia global e integradora para la inclusión social activa la planificación estratégica deberá tener una visión interdepartamental integrando a su vez a las instituciones y entidades y colectivos del sector para terminar algo

el apoyo al emprendimiento es importante para nosotros elaborar una estrategia global para el fomento de la educación emprendedora

y la propia actividad emprendedora para que se generen nuevos servicios y bienes que mejoren el bienestar de la población

económica contribuyendo a la creación de puestos de trabajo y crecimiento del país el posicionamiento de euskadi como territorio emprendedor

atractivo para la creación de nuevas empresas abierto innovador y conectado con las regiones más emprendedoras del mundo es una cuestión desde nuestro punto de vista esencial instamos al gobierno

a generar al gobierno y al resto de las instituciones también a generar un alto nivel

y el apoyo a las personas emprendedoras destacando el papel que juega la creación de riqueza y empleo a través del emprendimiento en una sociedad próspera y solidaria

aquí hacerme una reflexión

en favor del espíritu emprendedor y en relación a estas últimas propuestas de resolución que planteamos sobre el emprendimiento

son personas algunas mejores otras no tanto quizás

básicas tienen visión de oportunidad

necesidades en su entorno y las convierten en idea de negocio y muchas veces las convierten en su propio sueño tienen

y tienen capacidad de asumir riesgos son capaces de comprometer su tiempo y su patrimonio patrimonio que en muchas ocasiones no tienen y qué nos solicitan a las instituciones los emprendedores

que hagamos trámites más sencillos que les demos asesoramiento que creemos plataformas foros

que creemos esos foros de puesta en común ellos lo hacen ellos hacen el resto pero volviendo a la sensibilidad

respetando a estas personas y en este sentido es curiosa la metamorfosis que estas personas suelen sufrir

de ser valorados emprendedores a malvados empresarios en algunas ocasiones para algunos

son personas son personas que junto a otras personas tiran de este carro del empleo para terminar

un plan de choque a favor del empleo dentro de una estrategia